ideien lurraldea ere da legebiltzar hau esta cámara es también el territorio de las ideas es el espejo de la euskadi plural sí

mira hacia delante para seguir avanzando un país con la ilusión de aprovechar las oportunidades del momento de la crisis sí se sale con decisiones y con decisión la euskadi contemporánea siempre ha salido reforzada de las crisis que ha padecido

lo vamos a conseguir el pasado doce de diciembre me presenté como candidato a lehendakari ante esta cámara ayer se cumplieron nueve meses desde la conformación del nuevo gobierno y me van a permitir una

comienzo por retomar los tres mensajes centrales que expuse en aquel momento primero el contexto económico y social es difícil los dos primeros años de la legislatura dos mil trece y dos mil catorce

segundo el nuevo gobierno vasco afronta una situación complicada complicada porque los recursos disponibles son escasos con menos

mantener los servicios esenciales atender la demanda de más servicios sociales y a la vez emprender medidas de impulso económico

el nuevo gobierno inicia la legislatura en minoría el gobierno es consciente de la necesidad de propiciar un nuevo tiempo de acuerdos entre los partidos políticos el gobierno va a impulsar la colaboración entre todas las instituciones públicas bederatzi hilabete igaro dira eta indarrean diraute

soy muy consciente de las dificultades sí también de las oportunidades desde el gobierno impulsamos un clima político de diálogo quiero remarcar hoy

en la reunión que el día veintiuno de mayo mantuve con los representantes de las formaciones políticas con representación parlamentaria por primera vez todos los representantes nos sentamos en torno a una mesa nos encontramos juntos el partido nacionalista vasco eh bildu el partido socialista de euskadi el partido popular y upyd

un diagnóstico sobre la situación del país y los planteamientos de presente y futuro otorgo una gran trascendencia política a ese encuentro quiero decir que desde un punto de vista personal como vasco fue un momento ilusionante para mí sentí que podíamos dar inicio a un nuevo tiempo en este país

podemos retomar cauces para el entendimiento y la concertación sobre bases sólidas

podemos superar la política de bloques y de bloqueos podemos hacerlo primando la mirada al presente y al futuro aun teniendo cada cual su interpretación del pasado

vivimos un nuevo tiempo soy consciente de que como gobierno

algunos seguirán empeñados en desdibujarlo en la sola necesidad pero tenemos el deber y el mandato social de sentarnos para hablar y tratar de acordar un nuevo futuro para euskadi soy consciente de que al gobierno le corresponde la responsabilidad de propiciar fundamentar y desarrollar

y el partido socialista de euskadi un compromiso de gran entidad y alcance quiero aprovechar este momento para agradecer la visión y trabajo desarrollado por los responsables de ambos partidos quiero destacar esta actitud constructiva que insisto y lo hago ante las dos formaciones antepone los intereses de país euskadi mejora con este acuerdo y la sociedad así lo aprecia creo

creo que soy honesto en mi trayectoria creo en la necesidad de un clima que dé estabilidad a las instituciones públicas lo que es bueno y quiero para el gobierno vasco es bueno y quiero para el gobierno de las diputaciones forales y de los ayuntamientos

me he comprometido a favorecer la extensión de este acuerdo akordio politiko hau zabaltzen ahaleginduko naiz zabaltzeko konpromisoa hartzen dut

durante los tres últimos ejercicios el gobierno vasco había podido recurrir al déficit y al endeudamiento en una progresión que hoy no se puede mantener nuestro cálculo en diciembre del pasado año era que el nuevo gobierno contaría

dije que cualquier gobierno de cualquier color habría tenido que afrontar esta realidad

cifra insólita en la historia presupuestaria vasca no lo hemos ocultado

la única forma de ganarnos la confianza de la sociedad es asumir la realidad tal como es y obrar en consecuencia hemos hecho lo mismo que las empresas y las familias resistir en los momentos difíciles para poder afrontar el futuro

la recesión que estamos viviendo implica tensiones presupuestarias la crisis y el desempleo empujan al alza

que va a superar las previsiones iniciales el gobierno vasco ha solventado estas dificultades nos hemos empeñado en la disciplina presupuestaria

reitero disciplina presupuestaria nos hemos endeudado solo hasta el límite asumible sin riesgo de afrontar reequilibrios que lastren nuestra economía y sin riesgo de intervenciones externas

y está siendo duro para las y los consejeros en su primer año y lo va a ser presupuestariamente el próximo año reconozco su esfuerzo

su honestidad ante todos los agentes y colectivos que atendidos desde cada departamento se ven afectados por esta realidad

la crisis económica que padecemos es larga profunda y grave euskadi sigue a día de hoy en recesión tal y como estaba el pasado año

y austeridad asumimos las normas de estabilidad presupuestaria todo ello con el objetivo de recuperar la confianza y el crédito social

nuestro compromiso es mantener la prioridad económica basada en el rigor en el gasto corriente

nuestro compromiso es sentar las bases del crecimiento apoyar la formación el emprendimiento y la innovación mejorar nuestra competitividad fomentar la internacionalización

izan behar da hau nuestras propuestas están planteadas para favorecer la participación el gobierno tras un documento de bases entregado en abril a las formaciones políticas

una propuesta para suscribir un acuerdo interinstitucional para la revitalización económica y el empleo en euskadi

se trata de poner en marcha actuaciones y proyectos concretos en sectores importantes para nuestra economía valorados en ciento ochenta millónes de euros

que vamos a afrontar desde la acción concertada comprometimos prioridades comprometimos que las personas serían lo primero pertsonak beti lehenago pertsonak helburu garantizar y consolidar las políticas públicas para las personas que más lo necesitan este es el acuerdo interno del gobierno

conformamos un gobierno que se fundamenta en las ideas humanistas con un compromiso social nuestro compromiso es garantizar unos servicios sociales de calidad para todas las personas

está destinado a gasto social estamos gestionando el presupuesto más social de la democracia en euskadi

la sanidad la educación y la protección social son las prioridades de este gobierno nuestra prioridad es mantener un sistema sanitario público y universal

es garantizar un sistema de protección social para que nadie se quede atrás sanidad educación y protección social son nuestra prioridad son las herramientas políticas para garantizar la igualdad y la cohesión social nadie duda

y pese a discursos sesgados de la apuesta de este gobierno por garantizar los servicios públicos esenciales y de calidad hoy quiero anunciar que de conformidad con las prioridades marcadas en el plan de salud

medidas compensatorias de los gastos sanitarios el objetivo es garantizar la equidad en la salud de todas aquellas personas que se encuentran en situación

entre los colectivos destinatarios de estas medidas tendrán una consideración específica las personas jubiladas y pensionistas con ingresos inferiores

estas personas recibirán una ayuda económica para compensar con carácter retroactivo sus gastos farmacéuticos desde el día uno de julio del presente año

agindu genuen hemos reducido el sector público el gobierno ha tomado la decisión de aprobar un plan de redimensionamiento y racionalización del sector público es el primer plan de estas características comprometidos o comprometido por el propio gobierno el gobierno por decisión propia reduce su estructura institucional vamos a pasar de cuarenta y dos sociedades públicas a veintiocho

a ciento ochenta y nueve nunca antes se había tomado en este país una decisión de esta envergadura y alcance por primera vez tras treinta años de crecimiento continuo la estructura administrativa

hemos comprometido un ahorro de doscientos treinta y cinco millónes de euros este mismo año el gobierno ha querido predicar con el ejemplo nos corresponde analizar y mejorar la estructura institucional de euskadi

comprometimos plantear una revisión de mayor calado de la arquitectura institucional vasca

la ley de territorios históricos y la ley municipal pendiente desde el día doce de junio

en la que podremos avanzar también con la participación del gobierno hemos manifestado la disposición a aprovechar este foro para propiciar un acuerdo amplio

compartimos la necesidad de revisar la arquitectura institucional la necesidad de reformar la administración pública para hacerla más competitiva y eficiente

herri izaerako erronka moduan he presentado en primer lugar las medidas para reactivar la economía segundo

un plan enmarcado en la estrategia de reactivación económica cuatro departamentos del gobierno elaboraron este plan de choque que contiene sesenta y cinco iniciativas orientadas a garantizar

y tercero medidas de garantía juvenil medidas específicas este es uno de los objetivos prioritarios del gobierno para esta legislatura vamos a desarrollar

en colaboración con los centros educativos vascos a este empeño responde la dotación de quinientos becas de internacionalización para la formación con prácticas en el extranjero a este empeño responde el programa lehen aukera de primera experiencia laboral dotado este año con dos coma cuatro millónes de euros y dirigido a mil doscientos jóvenes formados en centros universitarios de formación profesional el acuerdo para el programa de junior cooperativas o las ayudas para la contratación de jóvenes en prácticas en centros de trabajo fuera de nuestro territorio

son programas puestos en marcha que vamos a ampliar el próximo año este es el modelo de gobierno principios

el gobierno afronta la puesta en marcha de estas propuestas desde el compromiso desde la convicción de que es necesario reforzar la confianza de la sociedad en la acción política

definir con claridad las prioridades elegir prioridades ha significado tener que afrontar compromisos anteriormente adquiridos y aplazar periodificar y redimensionar algunas actuaciones del gobierno

no lo ocultamos no hemos podido mantener la dotación en el ámbito de la cooperación al desarrollo ni en varios programas de investigación e innovación

no hemos podido responder a determinadas subvenciones en los ámbitos del turismo la promoción comercial la cultura el sector terciario

necesita de una reflexión profunda en la atención institucional no hemos podido acometer determinados equipamientos e infraestructuras públicas

ante una sociedad que íntimamente se siente orgullosa de que ahora atendamos lo prioritario el sentir mayoritario en la sociedad nos emplaza también

rigurosa de los recursos públicos una atención especial a las personas más afectadas por la crisis y el desempleo son exigencias que asumimos

hemos cumplido con los términos de la petición que el pleno de este parlamento aprobó el pasado catorce de marzo

antes de finalizar el curso un plan que incluyera tres ejes prioritarios primero avanzar en una política de memoria verdad justicia y solidaridad sin equiparar ni excluir ninguna vulneración de derechos humanos

política y social del terrorismo segundo contribuir a consolidar de modo definitivo la desaparición de eta

la convivencia y la normalización social tercero promover un espacio de encuentro social y democrático

en que el respeto a las reglas de juego la pluralidad y la defensa de todos los proyectos políticos democráticos convivan con normalidad me gustaría

es una propuesta que no desdeña el trabajo precedente sino que lo pone en valor el plan detalla dieciocho iniciativas de ellas doce

desarrolladas en anteriores legislaturas por el gobierno y por este mismo parlamento el plan de paz y convivencia procede de una tarea compartida y apuesta

la crisis económica ha puesto al descubierto las carencias del modelo de estado se ha agotado el café para todos nos corresponde realizar una nueva propuesta plantear un nuevo modelo de relación para el futuro nos encontramos en un nuevo tiempo un tiempo de decisión del futuro de euskadi

el modelo de estado autonómico se ha debilitado el marco europeo ha cambiado formamos parte del euro y del sistema financiero europeo un sistema que reconoce nuestro modelo genuino de concierto económico la realidad social económica

en nuestro entorno es diferente a la del pasado reciente y es cambiante nuestra propuesta es aprovechar este reconocimiento como una oportunidad la oportunidad de actualizar nuestro estatus de autogobierno sobre una base acordada a nosotros y nosotras

nos corresponde alumbrar una nueva propuesta que dé entrada y salida a todas las aspiraciones políticas propongo abordar este reto tomando como base tres principios el principio de la pluralidad la participación de todos los grupos parlamentarios garantiza este principio

nuestro compromiso es abordar este trabajo desde el rigor técnico y las razones jurídicas de forma que el debate de calidad favorezca el acuerdo

la insatisfacción con nuestro nivel de autogobierno tiene menos que ver con la literalidad de los textos y más con un desarrollo que no ha estado a la altura de las expectativas de bilateralidad e imparcialidad

podemos avanzar en un proyecto político y jurídico compartido

este es el lugar y este es el momento el procedimiento de trabajo requiere altura de miras requiere un análisis sosegado y sopesado de todas nuestras aspiraciones desde el respeto y la reciprocidad

el ideal es alcanzar un lugar en el que podamos encontrarnos satisfechos como resultado de un intercambio de propuestas y compromisos de un debate de razones ponderadas con equidad este es el reto que propongo en esta cámara representativa

creo en el acuerdo entre diferentes creo que ese acuerdo se debe acometer aquí creo que se puede sustanciar en esta legislatura mi compromiso y el compromiso del gobierno es propiciar el clima favorable

para que seamos capaces de articular una nueva propuesta de futuro político para euskadi bigarren zatian

nuestra economía se ha visto condicionada por las dificultades de nuestros principales mercados y especialmente

crisis económica española que este año tendrá una caída

la realidad es que el año se cerrará con la tasa de paro situada en el catorce por ciento

esto supone que el número de personas desempleadas se incrementará reflejando la gravedad y profundidad de la crisis y su afección al empleo el año pasado perdimos treinta mil empleos este año vamos a perder

tal y como adelanté la realidad es que hoy

la realidad es que uno de cada tres jóvenes que busca trabajo no lo consigue y que es dramática la situación del desempleo entre los mayores de cincuenta años

ante esta realidad nuestra misión ha sido mantener o contener mejor dicho el golpe hoy podemos decir que las aguas de la crisis están controladas estamos tocando fondo

tenemos ahora la oportunidad de iniciar el camino de la recuperación sin falsas ilusiones

este gobierno asumió con realismo la gestión de un presupuesto en periodo de prórroga

el proyecto de presupuesto de dos mil trece no pudo se aprobado por esta cámara es cierto pero el prorrogado a uno de enero

esto es disciplina presupuestaria el gobierno va a poder contar con una mayor capacidad de gasto

de nuestro objetivo de déficit y de deuda para el presente ejercicio en el marco de la normativa en materia de estabilidad presupuestaria esta oportunidad de acceder a un mayor endeudamiento nos va a permitir afrontar con menor tensión y sacrificio la situación de crisis

sino a flexibilización del déficit se dedicará a medidas de estímulo concertadas con los territorios históricos así como a planes comarcales de empleo

estas actuaciones nos dan la oportunidad de recuperarnos porque hemos actuado con rigor celeridad y resolución este es el camino para poder estar mejor

me van a permitir un apunte sobre el entorno del escenario en que nos encontramos un apunte sobre la realidad que nos rodea estamos asistiendo a procesos de cancelación o privatización de servicios públicos a propuestas de devolución de competencias de las autonomías al gobierno español por incapacidad de mantenimiento económico a aplazamientos continuos y paralización de iniciativas de inversión que se encontraban en marcha

al recurso constante al fondo de liquidez autonómico para atender pagos de la gestión presupuestaria correspondiente

en nuestro entorno una realidad que nada tiene que ver con la gestión pública en euskadi al revés aquí queremos mantener la solvencia hemos garantizado el compromiso con la consolidación fiscal sobre esta base de rigor y responsabilidad en la gestión pública asentamos ahora

expectativa cierta de un horizonte mejor no estamos bien pero vamos a estar mejor es obvio

no se logrará sin más ni más estos son los datos primero la evolución positiva de las exportaciones euskadi ha cerrado el primer semestre con un incremento del dos coma cinco por ciento en las exportaciones y ha alcanzado la cifra récord

es previsible que esta tendencia se pueda mantener o incluso mejorar durante todo el año

segundo el cambio de tendencia en la evolución del producto interior bruto en el segundo trimestre del presente año se ha producido un cambio de tendencia en la tasa interanual del pib en euskadi este punto de inflexión se produce por primera vez

de descenso progresivo la economía vasca ha bajado solo un cero coma uno por ciento en el segundo trimestre

la mejora de la economía europea en particular de francia y alemania entre estos dos países acaparan más de un tercio del destino potencial de nuestra actividad económica

y cero coma cinco por ciento va a tener una traslación directa en la mejora de la economía vasca

la positiva evolución de la recaudación en las haciendas forales los indicadores fiscales de agosto con un incremento del tres coma sesenta y ocho por ciento ponen de manifiesto el cumplimiento de las previsiones la reforma fiscal que emprenderemos en los próximos meses nos permitirá obtener incrementos en la recaudación a lo largo de la legislatura esta reforma no tendrá incidencia

euskal gizarteak bakea eta bizikidetza desiratzen ditu la mayoría de la sociedad vasca aunque quizás de manera silente nos demanda

y legarla a las generaciones futuras nos corresponde predicar con el ejemplo ante la sociedad por este motivo apoyo y apoyamos

de este parlamento necesitamos herramientas y espacios para gestar

el plan de gobierno es una herramienta y la ponencia parlamentaria es un espacio un espacio siempre abierto siguiendo con el diagnóstico de la situación

tengo que comenzar por reconocer que tenemos mucho trabajo por hacer vamos a seguir insistiendo para superar la atonía con la que nos encontramos los temas planteados por parte de la representación del gobierno vasco en la relación bilateral y pendientes son de calado

la relajación en el objetivo de déficit nos marca el camino para la necesaria concertación de los nuevos tributos y el acuerdo del cupo

en este acuerdo bilateral es necesario recuperar el respeto institucional iniciativas

la ley de costas la acción exterior la reforma de la administración local

nos conducen a un tensionamiento permanente de las normas de la bilateralidad en el ámbito de la convivencia nos corresponde tejer una relación de mayor complicidad

de forma más eficaz a la realidad que vivimos las razones para encerrarse en el inmovilismo de la política penitenciaria y las apelaciones a ilegalizaciones de formaciones políticas no son fáciles de entender

es un foro en el que debemos avanzar desde el acuerdo contamos con mecanismos para resolver estas cuestiones desde el diálogo y la negociación vamos a seguir apostando

bilateral por convicción y por eficacia hemos vivido momentos históricos más comprometidos hoy vivimos

y quizás podamos facilitar la interpretación hablando de adecuación

este nuevo escenario nos demanda un acuerdo tenemos mucho que avanzar cierro esta segunda parte con los ejes de la estrategia del gobierno he dicho que ante los momentos más duros de la crisis hemos mantenido el golpe en estos nueve meses el nuevo gobierno ha mostrado su estrategia sí afianzar los cimientos

aplazar las obras de la fachada y la decoración apropiada a cada momento los pilares de nuestra estrategia son sólidos uno

ciento sesenta objetivos y seiscientos diez iniciativas para mil días que es nuestro contrato social nuestro acuerdo con la sociedad

contamos con un planteamiento claro en materia económica financiera y presupuestaria el cumplimiento de los objetivos de déficit así como a tenerse con absoluto rigor

son dos de nuestras prioridades más importantes tres contamos con la estrategia de reactivación económica y empleo para la legislatura

para el impulso de la inversión la industrialización la internacionalización y la innovación

para la reactivación de la economía vasca el crecimiento y el empleo es nuestra propuesta para un nuevo futuro económico para euskadi lau

diez pilares estratégicos de nuestro gobierno afirmados estos nueve meses programa de gobierno planteamiento económico y financiero realista

políticas públicas y de protección social planificación estratégica redimensionamiento público programa legislativo

modernización del país código ético y de buena conducta estos pilares conforman una base sólida

la recuperación de nuestro país soy consciente de que esta labor de cimentación no es por sí garantía de éxito ahora bien

sólida y asentada no se construye el país

es cierto que hemos necesitado tiempo tan cierto como que este tiempo ha estado bien invertido y no voy a referir que siendo un gobierno ex novo asumiendo la responsabilidad ante todo tipo de circunstancias en qué fechas en el plazo de tan solo nueve meses

en todo caso los colectivos y agentes afectados por ellos

el nuevo gobierno tiene una estrategia es capaz de responder a las preguntas básicas de qué cómo y cuándo el gobierno avanza sobre terreno firme este es el camino

un periodo clave para sustentar la recuperación de euskadi abordo la tercera parte de mi intervención

en estos nueve meses hemos puesto las bases de la recuperación hemos puesto las bases

institucional que ha comenzado ya a dar sus frutos hemos mostrado nuestra disposición incluyente para avanzar en el desarrollo humano y el crecimiento sostenible la palabra clave es confianza la confianza va a sustentar la recuperación y el crecimiento en euskadi la inversión la reactivación el crecimiento y la creación de empleo requieren confianza la recuperación se va a producir lo que se dilucida ahora lo que debatimos aquí es nuestra capacidad para fortalecer y animar esta oportunidad cierta de recuperación esta es la razón de la relevancia del acuerdo político y su necesaria extensión al ámbito institucional euskadi va a crecer

y lo vamos a hacer sobre una base sólida se trata de que activemos al máximo nuestras capacidades después de dos años de eufemísticamente decrecimiento

nuestra estimación es que euskadi puede llegar a alcanzar porcentajes de crecimiento del pib cercanos

la velocidad y amplitud de esta recuperación hitz emandakoa betetzen jarraitzea da gobernuak daukan lehen konpromisoa

ekimenak en la mesa de partidos del pasado veintiuno de mayo planteamos cinco ámbitos de trabajo conjunto para avanzar en los acuerdos de país en la situación que vivimos este es el compromiso político con mayúsculas

durante los últimos años el debate y la disputa pública sobre el ámbito de la fiscalidad se han situado por encima de las medidas a adoptar con una visión global ahora tenemos la oportunidad de articular una reforma fiscal consensuada y capaz de garantizar certidumbre a las decisiones

la reactivación económica y el empleo tenemos ante nosotros un horizonte más despejado porque el acuerdo que he comprometido desarrollar

facilitar crédito y ayudar a las empresas y crear empleo la reactivación económica es una prioridad política y también institucional desde el día ocho de mayo hemos propuesto a las diputaciones forales y eudel una actuación interinstitucional valorada en ciento ochenta millónes de euros para fomentar

en primer lugar clarificar críticamente el pasado lo que implica

justicia y reparación al padecimiento de las víctimas en segundo lugar propiciar un encuentro social para el futuro sobre bases éticas

y aplicarlo sobre las bases de los siguientes mínimos primero

el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas todas ellas merecedoras del derecho a la verdad la justicia y la reparación acuerdo parlamentario del catorce de marzo de este mismo año segundo

debe ser leído a la luz de este acuerdo básico nada en su contenido

podrá ser interpretado en el sentido de minimizar o mucho menos

o legitimar el terrorismo de eta o cualquier otra vulneración de derechos humanos al contrario se asienta en el reconocimiento de su injusticia

ni su letra ni su espíritu podrán interpretarse en el sentido

o de excluir a ninguna parte de nuestra sociedad del proceso de integración social y político que el objetivo prioritario de la normalización de la convivencia requiere

a pesar de la escasa receptividad que estamos encontrando en el gobierno español nos comprometemos a seguir buscando el diálogo y el acuerdo instamos al gobierno de mariano rajoy a actuar en esta materia y a hacerlo

también esto es un mínimo y el quinto acuerdo es la actualización del modelo institucional de euskadi hemos incorporado a la propuesta de acuerdo político la elaboración de un proyecto de ley municipal consensuado con eudel para su aprobación el año dos mil catorce

para lo que ya en el debate de investidura mostré mi disposición ahora nos corresponde mirar más adelante como he dicho con anterioridad

y el sistema de autogobierno planteamos la constitución de una ponencia que impulse este proceso de actualización tanto de relación interna como de relación externa este es el momento y este es el lugar para plantear negociar

vamos a reforzar nuestros programas de financiación en apoyo a la empresa

a través de líneas de avales y convenios con las instituciones financieras la participación de las sociedades de garantía recíproca y de créditos participados el instituto vasco de finanzas va a asumir instrumentos de financiación pública para impulsar nuestra acción al servicio de la promoción y el desarrollo económico

que se destinarán a avales y garantías para el apoyo a la actividad productiva el apoyo a la financiación es básico para el impulso de la reactivación

vamos a reforzar el programa de apoyo a la industria vamos a favorecer nuestros proyectos

automoción aeronáutica energía y bienes de equipo esta es la base del crecimiento de la economía vasca vamos a reforzar una

uno en colaboración con el sector privado y centros de investigación vascos vamos a conformar un consorcio empresarial que permita el lanzamiento de un proyecto industrial de envergadura

el objetivo es liderar la fabricación de aerogeneradores de última generación que tendrá un efecto arrastre en el sector vasco de componentes

vamos a atender a las empresas y sectores en dificultades para garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo pondremos en marcha catorce millónes de avales

el foro marítimo los astilleros y el gobierno ya está en marcha vamos a destinar otros cien millónes de avales extraordinarios para apoyar proyectos industriales que posibiliten el mantenimiento de nuestro tejido empresarial tres vamos a apoyar

de medidas que garanticen su viabilidad incentivar la participación de los trabajadores en el capital de la pymes y micropymes para reforzar

con la colaboración y participación del sector privado empresarial vasco

cinco vamos a aprobar un programa de apoyo financiero a la exportación de carácter específico para las pymes vascas seis

en colaboración con los agentes de la red vasca de ciencia y tecnología

sobre las que vamos a sustentar una estrategia global de relanzamiento económico a la que vamos a destinar

euskadi va a crecer estamos en la línea de poder superar el peor momento de la crisis

certidumbre y confianza para aprovechar las oportunidades de este nuevo tiempo este es mi compromiso ante esta cámara y ante la sociedad vasca ideas propuestas debate y acuerdos para crecer

estamos viviendo un momento crítico un momento de cambio

las razones son conocidas crisis económica globalización irrupción de la tecnología movimientos demográficos

cambio de valores sociales debilitamiento de la política euskadi está en un momento crítico porque tenemos también que afrontar

un futuro político para las próximas décadas ante este momento crítico necesitamos espíritu constructivo construir

levantar necesitamos espíritu positivo cuando iniciamos esta legislatura y me presenté ante este parlamento era consciente

lo hice convencido de que teníamos que sembrar una semilla de cambio en la política que se venía ejerciendo en euskadi convencido de la necesidad de superar

entendía que el gobierno en minoría podía propiciar el diálogo abierto y multilateral

les he transmitido mi satisfacción al reunir a todos los partidos políticos

mi satisfacción por la suma de pequeños acuerdos entre instituciones mi satisfacción por el último acuerdo abierto entre partidos

avanzado en crear un tiempo de acuerdos necesitamos más puntos de encuentro más concertación política e institucional más entendimiento más puntos de encuentro de negociación y acuerdo en el ámbito del diálogo social

un nuevo periodo de concertación un tiempo de acuerdos de país el país lo necesita y nos lo reclama así lo siento a pesar

debemos construir que ha crear fabricar levantar un nuevo tiempo de madurez política lo necesita el país y lo necesita la política

a la acción política y transmitamos a la sociedad su componente de servicio y compromiso público nos toca ejercer la política en este momento crítico debemos ejercer la política con espíritu constructivo construir

levantar un nuevo futuro económico para este país para garantizar el desarrollo humano y la cohesión social construir crear fabricar levantar un nuevo futuro en paz y convivencia además de pasar la página de la violencia de eta

y convivencia sean definitivas construir

fabricar levantar un nuevo futuro político compartido hace nueve meses me presente ante este parlamento con la responsabilidad un tiempo verdaderamente difícil con espíritu de resistir hoy me presento ante este parlamento con la ilusión de superar

con espíritu positivo euskadi necesita construir crear fabricar levantar euskadi y su futuro nos necesita